eta aldezteko muchas gracias
señora presidenta señores parlamentarios gracias también por haber permitido estos cuatro minutos de receso para poder llegar a

propio trámite en el propio debate

a la que hemos podido llegar con el grupo socialista traemos aquí una moción como consecuencia de una interpelación presentada a la consejera hace apenas dos semanas en la que

implicar al gobierno en ese proyecto trilingüe que se puso en marcha la legislatura anterior muchos centros están trabajando en ese programa de educación trilingüe la apuesta

es por una educación trilingüe que supere la batalla de los modelos lingüísticos y que nos

aportar a todos un camino de consenso en materia lingüística en la educación vasca para abordar los nuevos retos para

desde la escuela vasca las familias hoy las familias vascas estamos convencidos de que quieren para sus hijos al término de la

les garantice una capacitación lingüística en euskera en castellano y también en inglés esa es una demanda de las familias que se viene además detectando

ofreciendo en este momento programas de educación trilingüe aquellos centros que están dando importancia cada vez mayor al ingles desde edades tempranas son los que en este momento tienen

una mayor demanda y yo creo que son en este momento objetivo de

pensando en cuales van a ser las mejores oportunidades cómo van a poder prestar las mejores oportunidades y las mejores

para el día de mañana nosotros le interpelábamos a la consejera en esta misma cámara para saber exactamente cuál es la apuesta de este departamento y cuál es la apuesta de este gobierno en relación con el inglés

a las conclusiones de los trabajos ya son varios años afecta a varios cursos y a muchos centros educativos ese programa experimental

que un gobierno cuando presenta su programa sus objetivos y la consejera lo hizo también fija y por lo menos

cuales van a ser los impulsos que el gobierno va a incorporar

en su propia acción política y nosotros sorprendentemente vimos que en el programa del departamento en las explicaciones de la consejera no hay

vimos que los programas lingüísticos se aparcan que efectivamente

los condicionantes presupuestarios lo que van a afectar entre otras cosas los programas del departamento de educación van a afectar de manera grave a todo lo que tenía que ver con el inglés las becas la formación del profesorado y también a los programas específicos que tenían que ver

esa preocupación que no vemos que el pnv y el gobierno vasco quiera apostar en este momento por el inglés y nosotros le hacíamos esa reclamación creemos

creemos que el modelo el sistema trilingüe en la educación pueda abrir una etapa distinta

permitir que a través de la garantía y la autonomía de los centros a través de una apuesta clara también por el respeto a la decisión de las familias podamos arbitrar un sistema de modelo trilingüe que permita garantizar que cualquiera de las dos lenguas oficiales

o el castellano puedan ser lenguas vehiculares de la enseñanza

muy importante en la educación pero que también lo tengan de manera suficiente el castellano y desde luego se incorpore de una manera importante también el inglés creo que esa es una reclamación yo no quiero entrar en un debate en el que nos tiremos los trastos a la cabeza he preguntado a la representante

nosotros hemos alcanzado un texto de acuerdo que sometemos a la consideración de los parlamentarios

tiene que ser una apuesta de todos que la política lingüística en la educación tiene que ser algo que podamos compartir y creemos nosotros creemos que aquello que se planteó que se puso en marcha la legislatura anterior y

nos puede permitir salvando las conclusiones a las que se llegue finalmente con los trabajos al termino de este curso y a las consideraciones de los propios técnicos y los expertos que nos dirán exactamente cuáles pueden ser las debilidades y las fortalezas

real y verdadera a pie de cada centro nos puede permitir encontrar puntos de encuentro para garantizar derechos de las familias para garantizar además

yo hoy no quiero ir más allá en este debate simplemente aprovechando la presencia de la consejera quiero volver a instar al gobierno y a través de esta moción lo hacemos nosotros desde el partido popular a instar al gobierno a tener muy en cuenta exactamente

en todas las comunidades ya se están poniendo las pilas en relación con el inglés el otro día veíamos en los medios de comunicación cómo en cataluña ya

los responsables del departamento de educación

que van a exigir un conocimiento suficiente de inglés creo que en el nivel be dos para el acceso a la universidad creo que todas las comunidades autónomas

haciendo sus deberes el país vasco no se puede quedar atrás no podemos dejar al país vasco por detrás de las demás comunidades autónomas

en el inglés creo que esa tiene que ser una apuesta de país también el inglés en la educación creemos que es una apuesta de país y creemos que el gobierno es el responsable

esa apuesta y desde el partido popular se lo reclamamos hoy una vez más nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna zuzenketak aurkeztu dituzten

aurreko kontrol plenoan la incorporación del inglés señorías y señora consejera

es un desafío el gran desafío de nuestro sistema educativo eta hauxe da aurreko

erantzunez vamos a seguir trabajando por garantizar el derecho de las familias a elegir la lengua de estudio de sus familias e hijos

horaria actual tendría que reformularse qué quieren decir estas afirmaciones que va a seguir manteniendo los tres modelos lingüísticos este gobierno si esto es así no nos encontraremos en el camino pero tampoco se encontrarán con los agentes educativos y la comunidad educativa ya que todos ellos

es la búsqueda del acuerdo necesario para avanzar hacia el plurilingüismo desde un bilingüismo real y efectivo con el euskera como eje con soluciones realistas

porque tenemos un gran reto por delante lograr un plurilingüismo real en base al principio de convivencia lingüística e integración plurilingüe definiendo los mismos niveles competenciales de adquisición en las dos lenguas oficiales

en la tercera un reto de gran dimensión que no se conseguirá con pasos atrás las peculiaridades de la política vasca nos han llevado en demasiadas ocasiones a jugar a pequeña buscando acuerdos de mínimos

y que solo permitían mínimos pasos adelante sin embargo ahora tenemos un parlamento vasco cuyas mayorías hacen que los pasos

en la educación en moneda de cambio para otros objetivos besterik ez eskerrik asko

egiteko aukera no es ningún capricho ni fue capricho personal ni de un colectivo

el establecer un marco trilingüe de ninguna de las maneras

publicadas quieren que sus hijos adquieran una buena competencia en inglés y que lo hagan en el sistema reglado ochenta y uno por ciento de las familias vascas el documento de euskera veintiuno de la importancia del bilingüismo y de la importancia de introducir con carácter general la tercera lengua extranjera principalmente el inglés pero es más señorías

cuando hicimos la primera evaluación diagnóstica que medía el inglés los resultados de esa primera evaluación diagnóstica aportaban lo siguiente entre los alumnos que acudían a clases de inglés fuera de sus centros educativos

en primaria en cuarto de primaria había veintiuno puntos de diferencia veintiuno puntos de diferencia de doscientos cincuenta que es la medida de la primera evaluación diagnóstica y entre los alumnos que acudían a clases de inglés fuera de sus centros educativos había

pero saben ustedes quienes iban a clases de inglés fuera de sus centros educativos pues lo hacían un ocho por ciento del modelo a de la pública

obviamente este acudir a clases de inglés en academias

con mejores o peores notas en la materia se corresponde con un nivel socioeconómico y se corresponde con la necesidad que tienen las familias de que sus hijos mejoren en inglés y por qué tienen las familias esa necesidad de que sus hijos hagan inglés en los centros educativos

en una necesidad básica en un mundo globalizado igual que las nuevas tecnologías necesidad

es decir no es un lujo no es un lujo el impulso al inglés hoy pasa porque todo el mundo pueda acceder

porque todo el mundo todo el mundo al margen de su renta pueda tener unas estancias de inmersión lingüística en inglés al margen de su renta

a esa tercera lengua de una manera evaluada competente generalizada por lo tanto cuando ustedes dicen plurilingüismo qué quieren decir cuándo yo le oigo decir al lehendakari trilingüismo qué quiere decir cuándo no le oigo decir nada

sino sobre plurilingüismo qué quiere decir cuando leo en su programa de gobierno señorías en su programa

leo que quieren se pretende en educación un sistema sólido un sistema riguroso a salvo de cambios políticos coyunturales qué quiere decir

van a empezar de aquí en adelante o valen también los de detrás es decir esto es nadie lo comprendería el euskera no

para transitar en el mundo globalizado no basta

la lengua de la ciencia es el inglés y eso lo sabe todo el mundo en este país

y también lo sabe bildu también lo sabe bildu por tanto no entendemos en absoluto por qué esta marcha hacia atrás no entendemos por qué este gobierno con una vergonzante de decir no habla de trilingüismo no entendemos por qué no se sigue esa trayectoria y se habla de un sistema plurilingüe que trabaje también sobre la lengua del inglés principalmente oiga el trilingüismo a diferencia del plurilingüismo

ha de ser extensible a todos los centros educativos igual que lo ha de ser el euskera igual y además la tercera lengua extranjera trabaja

con mayor presencia por su situación de diglosia y del castellano por tanto no entendemos esta marcha atrás y esta marcha atrás nos permite decir

que no lo quiere en el sistema educativo vasco porque desde luego si por las cuentas que nos han traído hemos de fiarnos desde luego hay un retroceso de nada menos que del cuarenta y cinco por ciento del impulso y es más la formación de los profesionales está situada un noventa por ciento más abajo de lo que estaba como para que luego ustedes señores del gobierno nos vengan a decir que el trilingüismo no se puede establecer porque hay falta de formación de los profesionales

a ciento cuarenta mil quinientos euros en la formación de los profesionales obviamente

tiene que fundamentarse en la formación de los profesionales y en una evaluación rigurosísima una evaluación que está llevando en este momento nada menos

quién da más señora consejera quién da más

quién da más garantías para una evaluación rigurosa del marco de la educación trilingüe que está hoy en marcha hasta el año

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos efectivamente el señor oyarzabal nos trae un asunto interesante nos trae una consecuencia de una interpelación que se plantea como consecuencia de que ha habido un cambio de gobierno y como consecuencia de que este

se realiza esa interpelación y se plantea este interesante debate sobre el trilingüismo

ciertamente interesante sobre el que cabe pedir explicaciones claras y concisas al nuevo gobierno para saber a qué atenernos y qué es exactamente

que creo que es al fin y al cabo lo fundamental lo cierto es que en esa interpelación

por el señor oyarzabal la consejera de educación dijo algunas cosas como las siguientes decía la consejera de educación en esa interpelación

ni a que el alumnado tenga un conocimiento práctico de las lenguas oficiales a la finalización de la enseñanza obligatoria decía la consejera que la superación del modelo a está prevista en la propia legislación decía que

y así obtendremos conclusiones en relación con el número de horas impartidas en cada lengua en relación con las materias elegidas para impartir en una lengua

adquirido en cada lengua propuso la señora consejera

desde un bilingüismo real y efectivo con el euskera como eje con soluciones realistas y flexibles planteó la señora consejera dos tareas fundamentales a realizar por un lado analizar con mayor profundidad la información disponible y concretar por otro lado un plan de trabajo para el próximo curso que nos permita sacar mayor provecho a este proyecto y también en esa respuesta a esa interpelación del grupo popular que este gobierno apuesta por el inglés aunque no solamente por el inglés sino también otras lenguas como pueden ser el francés o el alemán en conclusión y en nuestra opinión y según lo que hemos visto en esa interpelación y según lo que hemos venido observando

las primeras intervenciones de este gobierno demuestran o transmiten que tienen serias dudas respecto al marco

el gobierno ha demostrado poco convencimiento al respecto por razones obvias es el gobierno vasco el que debe aclarar cuál es su apuesta y qué quiere y es lo que nosotros también aquí hoy le pedimos

estamos a favor del trilingüismo en la educación obligatoria y consideramos que es un objetivo ambicioso intentar conseguir que todos los alumnos vascos tengan unos conocimientos

y en inglés creo que obviamente no podemos olvidar ni obviar que el euskera y el castellano son las lenguas cooficiales en nuestra comunidad pero tampoco podemos obviar la extraordinaria importancia del inglés

la mayor parte de las relaciones internacionales y la lengua que permitirá a nuestros estudiantes

y también vital por eso no acabamos de entender que la consejera hablara

es cierto que el alemán es importante que el francés es nuestro vecino

cientos de millónes de personas en china y dependiendo para qué negocios o para qué estudios también son fundamentales o importantes otras lenguas minoritarias pero eso solo puede entenderse como una mera disculpa o un ejercicio de escapismo

hoy en el mundo la lengua de comunicación es el inglés y todas las demás son complementarias hay que estar muy ciego o tener muy pocos argumentos para defender una educación plurilingüe en general pero

o directamente denostar como hacen algunos el marco trilingüe que ya está en marcha y al que se han adherido ya un número muy significativo de centros

determinados obstáculos el ambicioso objetivo de impulsar la educación trilingüe choca con un obstáculo

insistimos en la pasada legislatura que es la capacitación lingüística de los docentes creemos que es ahí donde en este momento habría que hacer un gran esfuerzo y dedicar muchos más recursos económicos para conseguir que tengamos

que puedan impartir las distintas áreas en ese idioma pero este gobierno no está por la labor como se demuestra en el proyecto de presupuesto que ha presentado basta con ver las partidas destinadas a estos asuntos becas formación de profesorado

antes que en esta comunidad tenemos dos lenguas oficiales y que es importante garantizar un conocimiento suficiente y adecuado de ambas lenguas castellano y euskera

lingüísticos actualmente vigentes entre los que las familias deben poder optar libremente a la hora de matricular a sus hijos sin ningún tipo de presión ni chantaje es decir sigue siendo fundamental a día de hoy

elegir libremente lo que la ley supuestamente permite en resumen básicamente de acuerdo con la moción planteada por el grupo popular estamos también de acuerdo con la transaccional que ha firmado el grupo popular con el grupo socialista ya que recoge lo que nosotros también defendemos apoyo al modelo trilingüe

y apoyo a la capacitación lingüística de los profesores para terminar y en conclusión sí

y a la introducción del inglés sí a la capacitación idiomática de los profesores y sí a algo que nosotros consideramos muy importante sí a que se garantice en todo caso que cualquiera de nuestras dos lenguas y castellano puedan ser lenguas vehiculares en la enseñanza esto para nosotros es muy importante es un derecho de las familias es un derecho de los niños es un derecho de los jóvenes que ambas lenguas una y la otra puedan ser lenguas vehiculares en la

sabemos que estos principios sabemos que estas lógicas y razonables reivindicaciones especialmente la reivindicación de la libertad y en concreto la reivindicación de la libertad

de los nervios a los más talibanes lingüísticos del lugar en este caso representados especialmente por eh bildu pero es lo que

y lo que necesitan y quieren los ciudadanos vascos y nosotros lo seguiremos defendiendo por lo tanto todas estas propuestas todos estos principios libertad libertad lingüística que el euskera que el castellano

introducción del trinlingüismo introducción del inglés nos parece

votaremos la enmienda de transacción firmada entre el grupo socialista y el grupo popular nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandan

muchas gracias presidenta en primer lugar y empezando por el final agradecer al señor maneiro su apoyo a la enmienda de transacción

seguir manteniendo vivo este debate del inglés y del trilingüismo

curso parlamentario y yo creo que a lo largo de la legislatura en la medida

trabajar en esta dirección yo señor

en otras ocasiones cuestionar el modelo de implantación trilingüe que se puso en marcha ese modelo experimental

siempre su grupo me refiero al que usted pertenece ahora y el que coordina a bildu tiene más que ver con la batasuna que con el propio grupo de eusko alkartasuna pero ustedes siempre cuestionaron el modelo trilingüe porque

absolutamente trasnochado donde siempre han defendido teorías ya descartadas por cualquier en el que una lengua contamina a la otra y claro ustedes al final además de no respetar

en este momento se oponen a sumar nuevas herramientas nuevas herramientas que van a ser útiles que necesariamente pueden ser útiles al conjunto

piensan que el inglés hoy es un problema para el euskera y siempre cuando abordan

debate del trilingüismo siempre creen que el inglés y la introducción del inglés supone un problema para el euskera siguen machaconamente en el discurso

es enemigo del euskera como hace ya muchos años también

contaminaba el euskera y quisieron hacer una separación de centros y de aulas planteamientos que luego quedaron absolutamente aparcados porque eran inadmisibles

pero ese tratamiento de las lenguas yo creo que está superado y aquí lo importante es saber

que tiene el pnv que realmente es quien tiene la responsabilidad en estos años

un modelo que sea capaz de afrontar los retos que tiene el sistema educativo en el futuro y le escuchábamos a la señora mendizabal

no nos enteramos de nada más de lo que decía en las otras doscientos páginas no sé si era muy interesante pero vamos solo se ha quedado

referéndum en el dos mil quince no debía de haber nada más de

que este gobierno no tenga ese compromiso y no lo manifieste en su programa y que hablaba de excelencia luego nos ha dicho que también esos son los valores que forman parte de su proyecto de construcción nacional

hablando es de cómo conseguimos un sistema educativo de calidad eficaz acomodado a los tiempos y que sea capaz de

a los alumnos vascos las mejores herramientas para poder afrontar su vida el día de mañana yo creo que el problema es que todo lo supeditan ustedes y lo están supeditando en este momento y lo supeditaba la consejera

a las conclusiones del estudio pero no es un problema de conclusiones se puede discutir la fórmula de implantación

seguramente las recomendaciones del informe de conclusiones las recomendaciones en relación con cómo se puede acomodar adaptar ese sistema de implantación para que sea más óptimo pero desde luego lo que nadie discute es que el inglés es un eje estratégico de cualquier sistema educativo hoy

que es compartito por todo el mundo hoy y la cuestión está

en preguntarnos qué está haciendo el gobierno independientemente de cuales vayan a ser las conclusiones adelantarse a los acontecimientos y el problema es que vemos que el gobierno tendría que estar ampliando reforzando los programas de formación del profesorado apostando por los programas de inglés en todos los niveles de becas del inglés también y qué vemos que está haciendo todo lo contrario

se caen en los presupuestos del gobierno vasco a la mínima expresión no se plantean nuevos programas

para el inglés en la educación luego no solo no nos estamos adelantando a las conclusiones sino que lo que vamos a hacer es perder dos años o tres años en lo que tiene que ser

y termino señora presidenta esta es la reclamación que le hacemos desde el partido popular creemos que el gobierno se tiene que retratar no se puede poner de perfil no puede ser que llevemos ya unos meses y que

no solo prácticamente no se atreva a pronunciar la palabra trilingüismo sino que además se pone de perfil nos dice que ya llegarán las conclusiones y entonces ya nos contará cuál es

cuál es el programa del pnv cuáles son las intenciones del pnv en materia de inglés en la educación independientemente de cuáles sean las conclusiones de ese proyecto experimental

lo queremos ver con hechos con programas puestos en marcha ya que los podamos visualizar en los próximos presupuestos y desde luego de eso

usted nos dice que queremos programas monolingües que no queremos programas trilingües lo que queremos son niños vascoparlantes que le quede claro niños vascoparlantes plurilingües que hablen que hablen castellano y que tengan una buena competencia en una tercera lengua y si es posible una cuarta lengua también que le quede muy claro eso que eso es lo importante

y para eso hay que plantear cuál es el camino cuál es el método para conseguir eso y entonces hay una gran diferencia entre ustedes y nosotros es decir que en los objetivos ustedes no quieren que haya niños vascoparlantes plurilingües esa es la gran diferencia porque señora celaá usted decía lo mismo

su tiempo el ochenta por ciento hablando de lo que es el inglés no puede haber niños trilingües si no hay niños bilingües

por lo tanto lo que nosotros estamos planteando es niños bilingües euskara y castellano que son las lenguas oficiales de esta comunidad autónoma que son las lenguas oficiales me toca a mi es que son las lenguas oficiales de esta comunidad autónoma y planteamos que también tengan un nivel importante

los niveles que se tenían que tomar como referencia al finalizar la educación secundaria obligatoria que eran el be dos para el euskara el be dos para el castellano marco europeo de referencia y el be uno para el inglés

se los ventiló de un plumazo no me diga que no y usted ha venido aquí a hablar de niveles del inglés eso planteamos nosotros y se los ventilaron por lo tanto vamos a ser serios y vamos a centrar el tema en lo que entendemos nosotros que es el fondo

señor oyarzabal no se lee las recomendaciones de la comisión europea

y dicen clarísimamente las recomendaciones que la lengua minoritaria tiene que ser la que hay que reforzar pero si lo dicen ellos

pone clarísimamente nuestro objetivo es conseguir un alumnado euskaldun y plurilingüe es lo que está pidiendo la comunidad educativa y señor oyarzabal que me diga usted

nos decía también la señora celaá que con el euskera no basta

ustedes quieren plantear el inglés como el enemigo del euskera y esto no puede ser admisible

es pionera en la introducción temprana del inglés empezó hace muchos años se empezó hace muchos años por lo tanto qué me está diciendo

que en su ley pretende euskaldunes que sepan que tengan la misma competencia es lo que dice la ley que tenga la misma competencia en euskera y en castellano

y en los últimos años se ha planteado una competencia importante en una tercera lengua que puede ser el inglés o que puede ser el francés porque sabe bien que hay

como tercera lengua el francés

euskara es el centro del sistema y usted lo sabe y no tiene más que puntualizar en qué punto durante la legislatura pasada

todo el respeto a nuestros predecesores todo el respeto pero mire no se lo pensaba decir pero ya que usted se pone así mire usted

secuestrado y le digo secuestrado porque era así

bastantes ejemplares por no decir todos los de la edición en un garaje bien empaquetados se titulaba análisis de la educación bilingüe editado por el departamento en abril del dos mil siete era plenamente consciente de la cuestión de la que estaba usted hablando y abogaba páginas doscientos treinta y ocho y doscientos treinta y nueve

de graduación múltiple de los niveles lingüísticos de referencia con niveles altos con niveles intermedios y con niveles bajos nada de be dos para todos

que se aplicarían a cada alumno en función de tres parámetros lengua familiar fíjese usted lo que es esto esto es volver al año ochenta y tres con los modelos lingüísticos aquellos que salieron de la ley de normalización del uso del euskera

en aquella ley decreto de modelos parámetros lingüísticos que se aplicarían en función de la lengua familiar la lengua de interacción dominante en su entorno y la centralidad del euskera en la escuela libro

al garaje eso no salió y yo sé que nos lo han hecho porque lo pone allí eso no salió oiga eso no salió y sabe por qué no salió porque eso contradecía

lingüística porque lo que ustedes hicieron en lenguas fue política no

esa es la diferencia porque esto señora mendizabal

es una experimentación de tres años y cualquier persona es decir de evaluación cualquier evaluador sabe cuál es la diferencia

no se plantea como se planteó el modelo quinientos de la noche a la mañana

cuáles qué proceso de experimentación hubo en el modelo quinientos

y procedían de ambiente familiar castellano estaban aprendiendo o retrocediendo cuáles cuáles había ninguno

a la que podemos asistir aquí hay un proceso de experimentación perfectamente garantizado

y en las lenguas con la universidad de cambridge y oigo decir de manera

a la señora consejera decir que la evaluación no está garantizada quién da más tres años

y todos los centros que entraron en la primera convocatoria públicos y concertados repitieron todos en la segunda ciento dieciocho centros

porque no hicimos tercera convocatoria precisamente para obtener todos los resultados todos los resultados en tiempo y forma para poder exponerles a ustedes a todos ustedes y para que todos los grupos parlamentarios pudiéramos decidir una generalización sobre el proceso de experimentación

dicen ustedes norabide objetivos lingüísticos están en el curriculum

la experimentación es para saber cuánto hemos obtenido y se están obteniendo resultados muy muy favorables y por eso las familias lo demandan

establecerlo en términos del marco de referencia europea de las lenguas es que no tiene marcha atrás y si ustedes no lo quieren ver y si ustedes no quieren ver la sociedad

porque no es lo mismo estar hablando de plurilingüismo como hace el programa que yo sí me lo he visto como hace este programa que no habla ni siquiera

solo habla del euskera hablando de la universidad oiga si queremos estar en el campo de la ciencia hay que utilizar el inglés sí o sí pero no es lo mismo hablar de un plurilingüismo así vago difuso cada quien lo que quiera porque de nuevo entraremos en la brecha lingüística

que no se merece esta sociedad por lo tanto señorías mucho cuidado con la educación mucho cuidado con lo que estamos haciendo mucho cuidado y sobre todo los que son responsables no es lo mismo un trilingüismo pautado generalizable extensible científicamente garantizado

o cinco claro que se pueden hacer cómo no se van a poder hacer pero no todos y nosotros lo queremos para todos y esa es la diferencia y la derecha muchas veces lo queremos para todos queremos algo generalizable extensible de fácil acceso a todas las familias

señorías tengan ustedes cuidado porque esto es realmente un hito una cosa importante en la educación vasca que podemos hacer porque tenemos innovación bastante

y lo que sabemos ya de la primera convocatoria es todo ello
bueno y favorable muchas gracias eskerrik asko celaá anderea

importante en la enmienda de transacción cuál es el derecho del alumnado a tener un conocimiento práctico suficiente en ambas lenguas oficiales

se le ha olvidado al partido socialista en la enmienda transaccional le repito que se ha olvidado del derecho del alumnado a tener un conocimiento práctico

ambas lenguas oficiales que no aparece en la enmienda transaccional

jauna ha dicho usted que es un tema tan importante que lo tenemos que acordar entre todos pues claro que sí entonces

una iniciativa y no contase con el apoyo de una mayoría social y política por mucho que ustedes se empeñen

a qué están jugando el inglés ha tenido su sitio y lo va a tener y lo va a seguir teniendo no juguemos con una cosa tan seria esto es el parlamento y además

como el programa de gobierno del señor lehendakari o que cada parlamentario lea la prensa acerca de ese proyecto de gobierno

legebiltzarkideok señorías la moción que hoy debatimos es consecuencia de una interpelación planteada hace cuatro semanas en la que planteábamos nuestra inquietud por la atención de crónicos en álava

es una inquietud que compartimos los grupos de la cámara como se muestra en la proposición no de ley que debatimos conjuntamente a iniciativa del partido popular

pero nosotros nos hacemos eco de una inquietud que existe en álava y en especial en vitoria gasteiz

al gobierno vasco la necesidad de reorientar la atención sanitaria en una ciudad que había crecido de forma importante y que en consecuencia

debía prestar servicios a una población en la que iba aumentando el número de pacientes crónicos

adaptado a esa necesidad creciente en esta ciudad se plantearon diferentes soluciones

un tercer hospital y fue el último gobierno el que afrontó este problema e hizo una planificación sobre la asistencia sanitaria en la ciudad

en una ciudad que acoge casi el noventa por ciento de la población alavesa y que como único centro adaptado a esta necesidad tenía uno muy bueno sí pero a cuarenta kilómetros pasando por un puerto de montaña poco accesible en definitiva tanto para los pacientes crónicos

sus familiares y limitado en su capacidad así que el anterior departamento consideró necesario readaptar las infraestructuras actuales en la ciudad mediante la opción menos gravosa y más racional esta planificación suponía una mejora considerable de ambos hospitales

uno de ellos levantando edificios complementarios en el

y una readaptación rehabilitación del hospital santiago que no permite

es verdad que no fue una planificación pacífica hubo sectores de la ciudad que cuestionaban este modelo pero lo incuestionable era la necesidad de adaptación a la nueva realidad

menor coste posible arrancada la nueva legislatura este gobierno optó por paralizar ese plan sin ofrecer otro a cambio el argumento del señor consejero es que no se puede hacer un plan en quince días que es verdad

este nuevo gobierno no se estaba enfrentando a un problema surgido de repente como vengo relatando partía de una demanda basada en datos reales y que los gobiernos anteriores iban tomando decisiones sobre el hospital santiago

y completa que analizara la solución de un modo conjunto de hecho por ejemplo en el hospital santiago se tomaron las decisiones de eliminar los servicios de ginecología y pediatría duplicados

poca actividad en el hospital santiago por lo tanto este no es un problema nuevo y que lo normal es que cuando un partido se presenta a unas elecciones

lo normal es que se tenga una idea aún a riesgo de que deba ser modificada por los necesarios acuerdos políticos y sociales para llevarlos adelante lo que no es lógico

y la única que surja sea paralizar lo más sorprendente es que en esta serie de convocatorias públicas por parte del gobierno hayan incluido un programa para mil días

al menos para álava tampoco un nuevo plan funcional para álava

nos aseguró que el rediseño de la red de atención primaria de álava está en su agenda desde el primer día pero como digo en el compromiso

porque las infraestructuras que deja de levantar la sanidad pública las levantan desde la sanidad privada

y de las previsiones de aumento de crónicos la parálisis de hoy es concertación el día de mañana

hace falta que este gobierno se aclare con lo que quiere hacer con el modelo sanitario que ofrece a los vascos

de redundar en buenas intenciones en la calidad en la colaboración y otras palabras llenas de connotaciones positivas pero hay que ir a los hechos

el consejero reconoció en su respuesta a la interpelación y en comparecencia posterior que hay una necesidad para los pacientes crónicos de vitoria gasteiz

señaló y aceptó y añadió como receta

que no es la solución y que propuso que santiago y txagorritxu tengan indistintamente camas de agudos y subagudos

está la concertación esta opción a nuestro juicio no solo es un parche sino es una renuncia en toda regla a la estrategia de crónicos además creemos

puesto que propone para la solución de los enfermos crónicos precisamente la duplicidad

nosotros le reclamamos al gobierno una estrategia integral

queremos ser exactamente igual en vitoria que en donosti o que en bilbao que tienen un hospital específico para resolver los problemas de los crónicos

que ofrece a la ciudadanía de bilbao consultas externas hospital de día servicio de rehabilitación

y cómo no servicio de hospitalización exactamente lo mismo que ofrece

el antiguo hospital de amara hoy integrado en el hospital donosti

bilbaínos y donostiarras por tanto reclamamos para los vitorianos exactamente

adaptada a las circunstancias económicas actuales claro que sí pero sin renunciar a tratamientos integrales por eso

ponga en marcha un hospital de crónicos que ofrezca a los ciudadanos de vitoria los mismo servicios que ofrece por ejemplo santa marina

servicio de hospitalización consultas externas servicio de rehabilitación para tratamiento

los hospitales de agudos no están en condiciones de ofertar precisamente el otro día compareció en comisión de sanidad una representación

acoge a diferentes asociaciones de enfermedades raras y nos reclamaron una de estas cuestiones

es para curar la enfermedad sino para mantener un mínimo de calidad de vida eso lo recogemos también como reivindicación que habría que incorporar

por tanto volvemos a reconocer que la situación actual no permite alegrías ni infraestructuras nada de un tercer hospital

las infraestructuras sanitarias públicas ya existentes y subrayamos públicas

de asistencia sanitaria especializada de la población de la rioja alavesa

a la que como este debate es concurrente con la que proponer el partido popular sumamos la reclamación de que el plan funcional que deba readaptar el ya existente puesto que lo rechaza el actual gobierno pero que

a este parlamento y sobre todo para resolver las situaciones de álava las necesidades que presente un nuevo plan funcional

no queremos que se pare el servicio público de salud tenemos ejemplos próximos que los socialistas no queremos seguir no estamos planteando la situación de euskadi sino la de las otras comunidades autónomas hoy algunas en muy penosa situación por eso plantemos dar una solución integral y adecuada a un problema que responde a la demanda de los alaveses

tengo que decir que no estábamos lejos pero

que me ha resultado un poco insuficiente la enmienda que propone el partido

que nosotros demandamos precisamente como solución dentro de la estrategia de crónicos

sí recoge el compromiso de continuar con el hua y eso nos satisface puesto que habíamos oído en otros momentos una posible duda por tanto aceptamos

porque creemos que este plan funcional tiene que recoger la mejora de los servicios a los enfermos agudos la mejora en el sentido de la gestión evitar las duplicidades e incorporar algunos servicios hoy inexistentes

lo permite y un único hospital de agudos lo podría permitir y porque no se compromete con la estrategia de crónicos que es la principal preocupación de nuestro grupo

el pasado dieciocho de febrero para explicar las líneas maestras de su departamento este grupo el grupo parlamentario popular decidió presentar una iniciativa urgente para su debate en pleno

el consejero en su comparecencia señaló que era un tanto prematuro hablar de las inversiones hasta no tener el presupuesto cerrado pero que las previstas tendrían más necesidad económica de las que el parlamento le iba a conceder una vez conocidos los presupuestos y explicados en esta cámara

que esencial no son las inversiones en relación al hospital universitario de álava para este departamento y para este gobierno el presupuesto

y la cantidad prevista para el parking en superficie son

esas son las partidas en relación a las inversiones en el

con el objeto de revaluar la cartera de servicios para definir dónde se dejan las prestaciones además mencionó la intención de elaborar un plan director en relación a estas infraestructuras sanitarias el doctor arriaza que coordina el grupo de trabajo con los profesionales especificó que en estos momentos se estaba

el nuevo plan funcional porque ya había un plan funcional elaborado por el anterior ejecutivo y que posteriormente se elaboraría el plan director en donde se detallaría con qué estructuras o qué cambio de estructuras son necesarias para llevar adelante el plan director

importante que no se haga borrón y cuenta nueva y que en dichos planes los pendientes digo

eta tokien banaketarako proposamena las diversas declaraciones ya no solo por el consejero sino también por algún portavoz como el portavoz del partido nacionalista vasco en el ayuntamiento de vitoria que hay que precisar que fueron las primeras sobre la revisión del proyecto de ulua han ocasionado incertidumbres en las inversiones sanitarias en álava entre ellas el futuro hospital de crónicos

al futuro de la atención sanitaria en nuestro territorio para el partido popular

y prioritario que tiene que contribuir a mejorar la asistencia sanitaria de la ciudadanía alavesa y poner a álava de una vez por todas

de la sanidad vasca dando una asistencia

nos referimos a cuestiones concretas como a reordenar y a ampliar la oferta asistencial a eliminar duplicidades a ofertar nuevos servicios nuevas especialidades para mejorar la calidad asistencial

competitivos y dimensionados en definitiva mejorar tanto las necesidades hospitalarias de los enfermos agudos como solucionar el problema pendiente de hospitalización de los enfermos crónicos que actualmente se tienen que desplazar hasta el hospital de leza por carecer la ciudad de vitoria gasteiz

que ello ocasiona ya en su momento el partido popular defendió

en su momento la defendió en solitario la propuesta a la que luego se sumó el partido socialista en la legislatura pasada y actualmente parece ser que el consejero el nuevo consejero señor darpón también

la necesidad de contar en el futuro con una infraestructura de estas características concretamente el señor consejero manifestó que hay una necesidad de pacientes

a su vez se refirió a varias posibilidades una disponer de determinado número de camas específicas destinadas a atender a personas con enfermedades crónicas

o concertar camas de estas características en algunos de los centros sanitarios de vitoria gasteiz el consejero por tanto es consciente

porque así lo ha reconocido es necesario un recurso específico

de vitoria gasteiz en consecuencia no se soluciona el problema

indemorable diseñar una solución definitiva que todos sabemos y somos conscientes de que tiene que venir más pronto que tarde

tener una dotación específica para estos enfermos cuando hay que recordar que vitoria representa el ochenta por ciento de la población de todo el territorio alavés

con todo el perjuicio que ocasiona para ellos especialmente para sus familias hablamos de una infraestructura que preste atención especializada a las patologías crónicas que englobe la rehabilitación y cuidados paliativos actuaciones avanzadas en

por tanto señorías no hablamos de un hospital con solo camas para estos enfermos sino de modalidades asistenciales muy concretas

oferta ambulatoria en consultas para realizar la evaluación y consejo terapéutico hospital de día para procesos crónicos comunicación interconsulta remota atención domiciliaria

envejecimiento de la población y en consecuencia la prevalencia de las enfermedades crónicas llevan a adecuar o tienen que llevar a adecuar los sistemas sanitarios a la atención de enfermos con patologías

el setenta por ciento de las muertes se producen en pacientes con enfermedades crónicas el ochenta por ciento de las consultas en la atención primaria y el sesenta por ciento de los ingresos hospitalarios corresponden a enfermos con estas patologías es necesario contar con los dos dispositivos

y aprovechar sus respectivas capacidades y potencialidades pero a la vez es necesario diseñar nuevas dotaciones que engloben nuevos servicios y que en un futuro también en vitoria gasteiz como en otras

hablemos de ulúa comoun verdadero complejo sanitario

que se realicen se ejecuten entorno al hospital de txagorritxu como también

cuando señaló que la parte nueva obviamente tendrá que ir

leo textualmente contamos con las dos mismas infraestructuras hospitalarias de la década de los sesenta cuando la población se ha incrementado en estos cuarenta años en vitoria

personas el mismo consejero lo reconocía hace unas semanas en la comisión de salud y consumo

son las mismas que hace mucho tiempo todos tenemos el mismo diagnóstico parece ser ahora

otro consejero nacionalista pues no tuvo estas inquietudes y quizás en infraestructuras hospitalarias estamos como estamos por esa razón pero nosotros entendemos que el diseño de la sanidad en este territorio histórico de álava está pendiente es la asignatura pendiente y señorías la ciudadanía alavesa

no puede estar al albur de cuáles son los planes del gobierno de turno o que estos cambien según el color del gobierno creemos que es necesario un consenso un consenso político entre profesionales agentes sociales y también que se implique a la ciudadanía en el diseño de un proyecto de futuro para la sanidad en este territorio

entre ellos la de los enfermos con patologías crónicas en esta

un texto por mayoría de eh bildu y partido nacionalista vasco pero un texto en el que no van a estar

desde luego dos partidos igual también un tercero

a la reflexión de que desde luego hoy en relación a esta cuestión que era necesario un consenso amplio

consenso amplio y que el partido nacionalista vasco tiene el consenso con bildu con el partido socialista hemos llegado a una enmienda de transacción como ha dicho la señora roncal estamos cerca de un acuerdo pero finalmente no ha podido ser

derecho pero analizando también el texto concreto que se nos había planteado y que estamos

adolecía de muchas cuestiones concretas y como decía de una concreción que a nosotros nos parecía fundamental en esta cuestión estamos de acuerdo

que tiene que traerse un plan funcional pero esta parlamentaria en su iniciativa ya proponía

se tenían que recoger las inversiones y actuaciones realizadas hasta

en ese plan se tenían que mejorar las necesidades de los enfermos agudos es decir tenemos que ir a más en la sanidad alavesa y se tiene que responder a las necesidades de hospitalización y atención específicas que presentan los enfermos crónicos

porque actualmente no están cubiertas y en ciudades de nuestro entorno como bilbao y san sebastián están cubiertas con infraestructuras específicas

la ciudad de vitoria gasteiz no tenemos una infraestructura específica y eso hace que los enfermos crónicos y sus familias

que eso se concrete en una infraestructura específica para los enfermos crónicos y que ofrezca a este colectivo unos servicios porque no nos conformamos con habilitar o concertar camas con no sé qué centro o con habilitar camas en uno de los dos hospitales o en los dos como os dijo el consejero queremos una infraestructura específica para estos enfermos

consultas externas especializadas rehabilitación hospital de día y urgencias creemos que es necesario consensuar este proyecto ya lo he dicho en mi intervención

realizadas hasta la fecha y planifique las actuaciones e inversiones en el futuro tanto en el hospital santiago como en el entorno del hospital de txagorritxu que como dijo el doctor arraiza es el lugar es el entorno en donde se va a posibilitar que se hagan esas inversiones porque es donde crecer en definitiva creemos que planteamos un texto realista un texto que pone deberes a este ejecutivo que hemos intentado buscar el consenso pero por falta de concreción y de compromisos concretos no ha sido posible buscar finalmente ese consenso con el partido que representa al gobierno y finalmente

aprobado el texto entre el pnv y bildu pero vuelvo a repetir para nosotros hoy

batez ere ospitaleak baina ikuspegia guztiz integrala izan behar du porque araba es un territorio con un núcleo poblacional

de la mejor manera posible y entendemos que la mejor manera de dar solución a todas esas necesidades que se plantean sin duda es la elaboración de un plan funcional en este momento además creemos que para lograr que ese plan funcional sea útil y efectivo

de todas las partes implicadas hablamos de profesionales sanitarios de los grupos políticos de los sindicatos y otras instituciones aprovechamos para trasladar nuestro apoyo a los y las trabajadoras y comités de osakidetza que están llevando acabo diferentes

es indispensable recoger sus planteamientos y contar con ellos y ellas no se puede repetir lo ocurrido con el proyecto iniciado en la legislatura pasada un proyecto que no contó con el beneplácito de muchos de los agentes

y debemos evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir por otra parte hay que tener en cuenta que ya se ha realizado una inversión en el hospital universitario de álava

así como los recursos humanos necesarios para llevar acabo dicha

por lo tanto es imprescindible que a la mayor brevedad posible y así se recoge en la enmienda en el texto que hemos acordado se limita el plazo

se nos presente el plan funcional primero y posteriormente el plan director para poder debatirlo y hacer las aportaciones que consideremos el propio

parte del anterior que no será un plan cerrado que estará abierto a todo tipo de aportaciones nos alegra

para que sus palabras se materialicen en hechos señora roncal yo entiendo su preocupación por los crónicos por los subagudos

mucho empeño en este asunto a nuestro grupo también le preocupan los crónicos pero si estamos diciendo en las dos enmiendas además se recoge muy bien vamos a esperar a ese plan funcional y que tiene que ser un plan funcional acordado no tiene mucho sentido que pongamos ciertas premisas previamente que puedan dificultar o impedir el debate posteriormente por supuesto como siempre reiteramos el gobierno tiene que poner los medios necesarios para que se cumplan

pero siempre bajo un sistema sanitario público gratuito y de calidad

a ver cuál es la estrategia de crónicos que nos presenta el gobierno eta hori izango da lekua eta momentua eztabaidatzeko arestian

que respetar esa decisión que se ha tomado por parte del partido socialista y por parte del partido popular aunque no la compartamos precisamente por eso

para lograr este consenso que al cual hoy no hemos podido llegar

gracias presidenta el grupo de los socialistas vascos y el grupo popular nos traen un interesante debate

a los ciudadanos alaveses como es el asunto relacionado con las inversiones sanitarias en álava por lo tanto un

importante sobre el que seguirá debatiendo en las próximas semanas y en los próximos meses porque

como parece que estamos todos de acuerdo hay muchos problemas y asuntos que resolver

hay algunas cosas que son más complicadas de realizar en el pasado quizás pudieron solucionarse algunas de ellas pero

hay muy poco dinero para la mayoría de las cosas en todo caso este creo que es un asunto fundamental sobre el que deberíamos tratar a fondo para llegar no solo al máximo consenso como todos los grupos proponen sino a las mejores soluciones posibles

y se va agravar en el futuro inmediato un problema con la atención a los pacientes crónicos y dependientes en este diagnóstico creo que coincidimos todos

y el control con fármacos de enfermedades que antes eran mortales nos llevan a que miles de ciudadanos

sanitarios se trata de resolver el problema de la mejor manera posible con el máximo consenso haciendo bien las cosas evitando parches y también evitando soluciones cortoplacistas lo cierto es que en nuestro caso

afirmación que realizó el consejero en esta cámara cuando afirmó que serán los centros de atención primaria los que protagonicen el control del paciente crónico mayor y dependiente porque esto es exactamente lo que llevan haciendo los médicos y enfermeros de los centros de salud desde hace muchos años es decir son los médicos de familia y los enfermeros o enfermeras

crónicos son los que cada día reciben a estos

recetan sus medicinas los visitan en sus domicilios y cuando es necesario

a los especialistas o incluso tramitan su ingreso hospitalario por lo tanto esto ya se hace por otro lado y como aquí se ha dicho no se puede pretender resolver los ingresos hospitalarios derivados de estas situaciones de cronicidad y dependencia de todos los alaveses afectados con el hospital de leza también creo que en esto estamos de acuerdo su ubicación es inadecuada para la mayor parte de la población alavesa solo resuelve el problema para una pequeña parte de la población alavesa para los demás incluso es un problema por el largo desplazamiento que

todos y tampoco con concertaciones con parches cortoplacistas se puede resolver estos problemas

no decir nada como decir que vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo desde hace

con enfermedades crónicas pues efectivamente en txagorritxu y santiago es decir

este gobierno no tenga un plan más concreto sobre la materia parece que en algunas materias y también en esta parece que el partido nacionalista vasco llegó al gobierno de manera sorprendente cuando

por lo tanto creo que este gobierno debería tener ya un plan especifico pensado para resolver

este más allá de determinadas estrecheces económicas en las que nos encontramos efectivamente comprendemos las estrecheces presupuestarias el departamento de salud es uno de los departamentos que sufre esas dificultades presupuestarias pero a nosotros nos gustaría saber con claridad si prevé seguir con el proyecto de remodelación del complejo de txagorritxu con las nuevas construcciones previstas por el anterior o si lo descarta completamente o pospone querríamos saber si se piensa seguir con ese proyecto o se ha enterrado ya en un cajón y se va a otro modelo y exactamente

cuanto antes el anunciado plan funcional de álava como así parece que va

dos enmiendas no ha habido un acuerdo mayor por razones que un servidor desconoce quizás podía haber habido un mayor consenso pero lo cierto es que a día de hoy nos encontramos con dos enmiendas bastante parecidas tampoco vamos a engañarnos con algunos puntos incluso casi idénticos pero que en todo caso

y más concreta la enmienda transaccional firmada entre el grupo popular y el grupo socialista aunque tampoco vamos a oponernos a la firmada entre eh bildu

que es importante y así esperamos que suceda que se presente cuanto antes el plan funcional del proyecto de hospital universitario de álava y posteriormente el plan director

que defina como se va a ir ejecutando técnicamente el proyecto recogido en el plan funcional un plan funcional que tenga en cuenta lo hecho hasta ahora y resuelva

siempre el máximo consenso entre todas las partes implicadas creo que a día de hoy es lo más importante y en todo caso sobre este asunto seguiremos debatiendo en las próximas semanas y en los próximos meses nada más y muchas gracias

para decir que se han mencionado aquí en varias ocasiones la falta de consenso que hubo en la legislatura anterior

que cuantas veces vino este proyecto al salón de plenos

obtuvo mayoría absoluta obtuvo apoyo

absoluta de los miembros de la cámara por tanto no se puede desestimar que en la legislatura anterior no hubiera habido consenso es verdad que el pnv no estaba en ese consenso es verdad que el pnv trabajó en la ciudad de vitoria para organizar una contraopinión

pero en la cámara había mayoría absoluta como digo así que no se puede rechazar

hasta ahora vigente alegando falta de consenso por otro lado tengo que reconocer que

finalización durará será un largo proceso no hay que olvidar que el proyecto del hospital unificado en donosti el hospital donostia

es posible que la próxima cámara tenga otras mayorías tendríamos entonces que decir que las mayorías actuales no valen un poco de seriedad señores

bien por centrarnos de nuevo en el contenido

que nuestra preocupación fundamental por el desarrollo del hua se basa

en que el programa de gobierno no se compromete en absoluto con las infraestructuras sanitarias de álava tampoco el presupuesto del dos mil trece

presenta ningún compromiso y que también existe preocupación porque ha habido diferentes portavoces del partido que sostiene al gobierno que han presentado

por eso necesitamos cuanto antes el plan funcional y el plan director para tener definitivamente una idea de cuál es el proyecto del gobierno también tenemos que decir que nuestra preocupación es por la situación actual de los enfermos crónicos a los cuales se les ofrece

una cama de agudos en el hospital de santiago o de txagorritxu que todos nosotros sabemos que no es utilización de una cama de agudos equipada y sostenida para enfermos que requieren muchísimo más complejidad

que por lo tanto está utilizando indebidamente una cama

utilizando como digo una cama que es muchísimo más costosa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la utilización del servicio significa un mal uso porque está bloqueando una cama que está generando una lista de espera para los enfermos agudos por tanto creemos que es urgente

para resolver los problemas de los pacientes crónicos y que la solución mencionada en algún momento por el señor consejero tampoco nos genera tranquilidad porque habla de ingresos en ambos hospitales eso que el proyecto venía a resolver que era evitar las duplicidades supongo que no será mantener las duplicidades para los enfermos crónicos y evitar las duplicidades para los enfermos agudos por tanto decirle también a la señora angulo que esto no es una premisa que dificulte los acuerdos para nuestro

es una exigencia básica es una exigencia básica que haya un compromiso para resolver los problemas de los pacientes crónicos

dificulte no podemos hacer tabla rasa y decir que todo es de nueva situación y esperar con los brazos abiertos a que llegue el plan funcional y entonces ponerle las pegas no hay un trabajo ya realizado hasta la fecha hay un diagnóstico de problemas realizados hasta la fecha que de alguna manera condicionan

nada más que reiterar la necesidad de que venga cuanto antes el plan funcional muchas gracias eskerrik asko roncal andrea euskal talde popularraren ordezkaria

cuando hay poco dinero hay pocos ingresos hay que establecer prioridades es cuando los gobiernos tienen que establecer más que nunca las prioridades y tienen

que este gobierno no ha definido adecuadamente las

las inversiones previstas o las inversiones necesarias para tener una sanidad de calidad

de alguna forma se paralizan o no van al ritmo digamos previsto sabemos por otra parte que el proyecto anterior tenía defectos este partido los denunció denunció que no se implicó debidamente a los profesionales a los ciudadanos

denunciamos alguna que otra ocurrencia del anterior alcalde

el alcalde actual que hoy está aquí presente que entonces era jefe de la oposición del partido popular por lo tanto fuimos también críticos con algunas cuestiones de ese proyecto con la implicación debida de la ciudadanía y de los profesionales

apelemos al consenso y busquemos esos consensos que son necesarios para que un proyecto de esta envergadura salga adelante y hoy

este proyecto no sale con el consenso deseable o que hubiera sido deseable para un proyecto de estas

la iniciativa y la enmienda de transacción pero con el acuerdo de dos partidos y no es suficiente para un proyecto de esta envergadura

al consenso y plasmar en un punto concreto de la enmienda de

y luego no predicar con el ejemplo pues también parece que ese punto se va a quedar en papel

de gobierno y aquí nosotros no hemos cambiado de opinión el partido popular siempre ha defendido

luego la pasada legislatura a raíz del pacto del gobierno con el partido socialista este grupo puso encima de la mesa una infraestructura

se llegó a ese acuerdo ahora parece ser que el consejero el señor darpón cosa que antes no hacía el partido nacionalista vasco porque votó que no a una infraestructura específica para crónicos nos decía que no necesitábamos infraestructuras nuevas

nuevas infraestructuras que leza resuelve con dificultad las necesidades de los pacientes crónicos

del propio consejero pero me da la sensación que en este aspecto

hay diferencias ustedes en su enmienda de transacción hablan simplemente de resolver las necesidades nosotros vamos más allá decimos es que las necesidades de los enfermos crónicos actualmente en la ciudad de vitoria gasteiz no están cubiertas no están cubiertas como están cubiertas en otras ciudades

bilbao o san sebastían o en el territorio de bizkaia y de gipuzkoa

está el complejo amara es decir hay infraestructuras específicas

para vitoria una infraestructura una dotación específica para estos enfermos que actualmente

ello supone y el perjuicio que ello ocasiona a sus familiares y cuando lo he dicho anteriormente vitoria representa el ochenta y cinco por ciento de la población de todo el territorio alavés

ustedes plantean dar soluciones a las necesidades de los enfermos crónicos hombre faltaría más también hay una estrategia de crónicos

a desarrollar para dar respuesta a las necesidades de los enfermos crónicos pero es que necesitamos algo más porque tenemos las dos mismas infraestructuras hospitalarias

la diferencia y desde luego el partido popular no se va a conformar con habilitar camas en plantas

no porque estamos hablando de mucho más estamos hablando de rehabilitación de cuidados paliativos de telemedicina de teleasistencia de nuevas modalidades hospitalarias

de los hospitales o en las dos y por cierto concertar camas actualmente ya se conciertan no sé si el consejero se refería también a concertar mas camas en definitiva

queremos un verdadero complejo sanitario en esta ciudad y en esta provincia

que se denomina hospital universitario de álava con dos hospitales

que ese nuevo diseño necesario para la sanidad en álava mejore reordene

a las necesidades de hospitalización de los enfermos crónicos nada más muchas gracias eskerrik asko garrido andrea eh bildu taldearen ordezkaria den blanco andreak dauka hitza

señora garrido es curioso que nos esté pidiendo consenso que nos esté pidiendo consenso para llegar a un acuerdo sobre este texto cuando usted y yo sabemos por qué no se ha firmado este texto esta enmienda no se ha firmado porque haya habido un problema de contenido

porque ustedes unilateralmente han decidido que no quieren estampar su firma al lado de la nuestra entonces diga las cosas como son

es curioso ayer en una comisión de educación sí firmaron un documento con nosotros yo no sé si es que depende de los parlamentarios y las parlamentarias depende de que sea una comisión del parlamento o sea un pleno el pleno es más mediático e igual hay que escenificar otra cosa no lo sé es que nuestro grupo ha acordado esta enmienda por el contenido de la misma y no por intereses partidistas que parece que es lo que ustedes sí han hecho

simplemente quería decirle eso y me parece que debería haber sido usted más valiente y decir las cosas

supongo que lo seguirá desde otro punto agradecemos que no vote en contra de nuestra enmienda transaccional y yo ni siquiera a ustedes

señora roncal la moción es consecuencia de la interpelación en la cual usted misma

no le pedía que hiciera magia al consejero es cierto existen carencias actualmente en la

principalmente debido a la distancia al hospital de leza

fue que no se trabajó el debido consenso para un proyecto de estas características

los agentes sociales con otras personas o agentes

el plan funcional anterior no lo rechaza no lo rechaza no se ha dicho en ningún momento de hecho en la comparecencia que hubo en comisión se dijo que se iba a tomar lo bueno que había cosas en las cuales se iba a basar esta nueva propuesta el plan funcional se iba a basar en el anterior plan funcional

a que el plan funcional recoja la necesidad de poner en marcha una infraestructura específica para los enfermos crónicos nosotros entendemos que puede que sea así de hecho el consejero también lo reconoció puede que sea así puede que sea esa la solución pero en todo caso es una decisión que habrá que tomar después de llevar a cabo un proceso de reflexión y de planificación de lo que es el proyecto

en su globalidad la señora garrido

nuestro grupo cree que sí de hecho

de lo que va a hacer a corto plazo pero también a medio plazo y a largo plazo siempre yendo a la par

porque es verdad a corto plazo de la noche a la mañana no es posible construir un hospital es imposible

le olvida decir que en numerosas ocasiones una de las principales críticas que ha hecho usted precisamente al proyecto del gobierno anterior era

adolecía esa falta de consenso no nos creemos

por criterios políticos de determinados partidos políticos

en cuanto a upyd decía que los que llegaron de manera sorprendente

no planteaba hospital de crónicos igual no sé si se refiere a los que llegaron

que no se limita una mayoría política en esta cámara sino

más extensa por lo tanto terminar diciendo que este gobierno llegó hace cien días existía un plan funcional es verdad al final

se le exige a este gobierno que o solucione de un día para otro algo que estaba sin solucionar

se hubiese ejecutado el plan funcional anterior de un día para otro no se hubiese construido un hospital para subagudos diez años por eso diez años mientras tanto pues había que tomar otra serie de medidas especialmente lo que le pedimos al señor consejero es que las presente que las proponga

en definitiva que creemos entendemos que esta falta de consenso se va a poder solucionar y que intentaremos trabajar para ello y en ese sentido le vamos a solicitar al departamento de salud también que ponga todos los medios

gracias presidenta una vez más nos toca hablar de los ayuntamientos y de la defensa de la autonomía municipal

seriamente cuestionada por la reforma de la ley de administración local que impulsa al gobierno de mariano rajoy una reforma que los socialistas entendemos como

que arrebata competencias y capacidades de actuar a los ayuntamientos que supone dar un paso más en el desmantelamiento de servicios públicos

de la política y sus instituciones algo muy parecido a lo que ya hizo la señora cospedal en castilla la mancha retirando el sueldo a los parlamentarios

en el conjunto de españa y afecteigualmente y de manera negativa al futuro de los municipios vascos

la presidenta de eudel ha llegado a afirmar que la reforma de la legislación local tal y como está planteada pone a los ayuntamientos a los pies de los caballos

y los socialistas compartimos plenamente estas afirmaciones por eso precisamente pensamos que los partidos y las instituciones vascas deben dejar oír su voz

exigir al gobierno de mariano rajoy que retire un anteproyecto que atenta contra la autonomía local que devalúa la capacidad política de los ayuntamientos y que además cuestiona seriamente las competencias de nuestro autogobierno y para exigir también al gobierno vasco

y traiga a esta cámara un proyecto de ley municipal como eudel le está pidiendo reiteradamente y que lo haga a la mayor brevedad posible objetivos ambos

pensamos que han sido alcanzados a través de la enmienda transaccional que hemos firmado con eh bildu y con el grupo nacionalista y de la cual nos encontramos satisfechos en ella en primer lugar

de forma tajante la absoluta importancia de los entes locales y su papel trascendental en la arquitectura institucional de ese país en segundo lugar se solicita la retirada del proyecto de ley al gobierno de españa y al mismo tiempo se asume un compromiso para que el gobierno vasco remita a la cámara

en un tiempo bastante más razonable que el que inicialmente manejaba el grupo nacionalista en su enmienda es verdad que no se recoge la pretensión inicial del grupo socialista

antes de que finalice el actual periodo de sesiones pero se han acortado sustancialmente los plazos que el grupo nacionalista planteaba año y medio para dejarlo en un año nos felicitamos de que el partido nacionalista vasco haya entendido

que haya entendido que los ayuntamientos vascos toca defenderlos ahora y no cuando sea demasiado tarde porque es aquí y no en madrid donde tenemos que decidir el marco legar de nuestros ayuntamientos

que para algo las tenemos en la enmienda transaccional se hace también una referencia expresa a la resolución del congreso de los diputados

políticos del congreso de los diputados excepto el pp en el que se hace también expresa referencia a la singularidad foral que entendemos que ampara también a los ayuntamientos vascos por tanto nos felicitamos

entre otras cosas a nuestra perseverancia una ley como la ley municipal tantas veces reclamadas por los ayuntamientos tan necesaria para completar el marco institucional del país

en este parlamento tenga en este momento plazo fijo para poderse presentar y para desarrollar con esa ley las políticas sociales que esta sociedad necesita el grupo socialista va a estar muy vigilante para que esos plazos se cumplan y para que el gobierno vasco

dispone de tiempo más que sobrado para hacerlo a poca voluntad política que tenga para sacar esta ley adelante porque en este caso no parte de cero teniendo en cuenta que ya hay avanzado en esta materia que es importante no tiene por tanto que esforzarse demasiado para remitir a la cámara un proyecto de ley municipal porque le hemos dejado ya el trabajo hecho teniendo en cuenta que existe un texto legal con abundantísimos puntos de consenso con los ayuntamientos vascos pactados en su día con eudel

con la resolución de la comisión arbitral que dejó claro que no había invasión de competencias de ningún género en aquel texto como arguyeron inicialmente las diputaciones forales

a esta cámara el anterior gobierno que es una de tantas buenas herencias que este gobierno ha dejado al país y pueden estar seguros señores del grupo nacionalista de que no vamos a poner ningún tipo de impedimento

no alegaremos ningún derecho de propiedad intelectual y creo que se lo ponemos en bandeja para que ponga en marcha lo antes posible ese proyecto de ley aspiramos a que el gobierno vasco sepa estar esperemos que lo esté a la altura de las circunstancias

a los problemas que afectan a los municipios vascos municipios vascos

por ciudadanos y ciudadanas militantes del partido nacionalista vasco y que comparten en gran medida aquel texto que se presentó en fin nos alegramos

haya abandonado una especie de ambigüedad que le hacía deslizarse por una práctica confusa de modo que mientras que sus representantes en madrid tronaban contra las disposiciones legales del gobierno de rajoy aquí en euskadi se mostraban ustedes bastante más sumisos con sus dictados hasta el punto de decirnos que la ley municipal no podía llegar la parlamento porque había que esperar

de la ley de administración local que estaba poniendo en marcha el gobierno de rajoy nosotros seguimos pensando que no hay que esperar a lo que nos digan desde madrid para ejercer

porque pensamos que las competencias no hay que pedirlas y exigirlas constantemente sino ejercerlas que es lo lógico y lo deseable y queremos que el gobierno vasco las ejerza

que creemos irresponsable en la anterior legislatura no me resisto a recordar

una ley municipal funcionando si no se hubieran practicado determinadas tácticas de obstrucción por parte de las diputaciones forales que fueron dilatando y retrasando permanentemente

un proyecto de ley municipal que remitió en una iniciativa el grupo

si no hubiera habido un afán de paralizarlo por parte de algunos partidos políticos de esta cámara en cualquier caso no es mi intención recrearme en el pasado inmediato

y en el compromiso con el trabajo con nuestros ayuntamientos que creo que hemos

en la enmienda transaccional que hemos pactado con eh bildu y con el pnv es importante en cualquier caso que tengamos en cuenta que por desgracia hemos perdido mucho tiempo en este país más de tres décadas esperando una ley municipal esperamos que esta vez sea la de verdad sea la buena y creo que es bueno

los errores del pasado aunque solo sea para no volver a repetirlos muchas gracias eskerrik asko pastor jauna eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena